reconocida desde el punto de vista jurídico y que no depende su oficialidad del castellano a diferencia de lo que plantea el señor isasi que en su

el euskera no se define desde el punto de vista jurídico por una oficialidad subordinada por eso apostamos por una

y equitativa entre el euskera y el castellano parafraseando algunas de las ideas vertidas por la consejera de educación política lingüística

en una interpelación realizada por xabier isasi en el pleno de control

sin duda dedicarle recursos porque mejora notablemente la cohesión social del país y aleja consecuentemente el peligro de aparición de comunidades estancas y enfrentadas

en hacer a los ciudadanos las cosas más fáciles en relación con el euskera y siempre teniendo muy presente

escrupulosamente la legislación vigente desde ese marco

no detectamos por ningún lado ninguna situación de represión

este escenario que dibuja la iniciativa de eh bildu está fuera de la realidad

inoiz baino baliabide gehiago bideratu dira no son mis conclusiones sino las vertidas por el consejo asesor del euskara en las bases para la política lingüística

aprobadas a principios del dos mil nueve que me parecen fundamentales recordar y reintroducirlas en el debate que eh bildu propone con su iniciativa pero a su vez hemos de decir claramente que no puede hablarse de normalización lingüística y sin responsabilidad individual y aunque a muchos les da miedo dejar en manos de la responsabilidad o elección la opción lingüística yo creo que es precisamente al contrario no hay normalización sin democracia y democracia quiere decir que hay que respetar todos los derechos luego también los derechos lingüísticos toda política lingüística en nuestro caso en euskadi tiene que tener presente que si quiere conseguir que la parte de la población castellanohablante se interese por el euskara y la haga suya

la lengua materna de esos ciudadanos y a partir de ahí empezar a plantear las cuestiones que se quieran hizkuntza eskubideetaz hitz egiten dugunean

el problema es atribuir a las lenguas rasgos que no les corresponden a ellas como tales sino a los hablantes de las mismas toda política lingüística sigo recordando las conclusiones del proceso de euskara veintiuno sea del tipo de sea

el uso del euskara se afianza sobre la voluntad espontánea del hablante voluntad

dominando incluso el euskara opta por utilizar otra lengua la política lingüística

y la progresividad debe ser flexible ponderada de forma que no se perciba como una agresión y siempre

evidentemente la izquierda abertzale no aprobó ninguno de los documentos

algunos pasos o veinte pasos más por delante que otros intentando imponer sin convencer y tirarán del carro e intentarán acercar al resto hacia ellos como es el caso

titular bat daukazuela la ley del euskera no garantiza o no da garantía jurídica eta horretan ari zarete

presidenta señoras y señores parlamentarios señor isasi un planteamiento innecesario de moción por qué por reiterativo y

lo que usted solicita en la moción está garantizado está generalizado políticamente y está desarrollándose a velocidad de crucero en esta legislatura con la aplicación de qué de muchos recursos públicos

de muchos organismos de muchos planes de muchas agendas de estrategias de evaluaciones de memorias

y los hemos visto en muchas iniciativas parlamentarias

incluso con un pleno monográfico que usted propició hace poco más de un año y que en teoría

debates sobre la actividad política en el ámbito de la normalización del uso del euskera

de cultura y política lingüística para una pretensión suya qué pasa fue insatisfecha

todo lo que usted solicita se está haciendo y se está garantizando a veces

analizar algunas de las políticas en relación con la política lingüística y las duplicidades pero bueno en cualquier caso está garantizado está generalizado

se cumple y también con normalidad se cumple por el delegado por la delegación del gobierno léase usted

barra mil novecientos ochenta y dos de normalización del uso del euskera pero

pida que se cumpla la ley vasca vigente

la ley el artículo ocho de la ley diez barra mil novecientos ochenta y dos ley básica de normalización del uso del euskera dice toda disposición normativa

que emane de los poderes públicos sitos en la comunidad autónoma del país vasco deberá estar redactada en forma bilingüe a efectos de la publicidad oficial dos todo acto en el que intervenga los poderes públicos sitos en la comunidad autónoma del país vasco así como las notificaciones comunicaciones administrativas deberán ir redactadas en forma bilingüe salvo que los interesados privados elijan expresamente la utilización

ni la delegación del gobierno ni los ayuntamientos son interesados privados son instituciones públicas o sea que en ese sentido

es cumplir la ley diez barra mil novecientos ochenta y dos

señor isasi uno de los consejeros que más comparece aquí en este parlamento es el señor baztarrika el consejero de política lingüística

intervenciones parlamentarias con estrategias con planes con evaluaciones con presentación de actuaciones de subvenciones de esos informes jurídicos a los que

diecinueve comparecencias últimamente algunas a petición suya

pero vamos a ver señor isasi de dónde detraemos más dinero

de la asistencia sanitaria domiciliaria de los programas para el empleo de dónde más

se plantearon la cantidad de actuaciones que había en relación con el desarrollo de la normativa vigente en relación con el uso del euskera y

el impulso del uso del euskera desde luego desde nuestro punto de vista forma parte de todas las prioridades de los planes gubernamentales vigentes ya le he dicho las comparecencias

y de los forales y de los municipales pero si lo vemos y lo conocemos si no hay más que ver cuáles son esos planes

usted señor isasi trata de dibujar permanentemente ese panorama

irreal ustedes lo único que quieren es presionar y asfixiar a una sociedad que quiere moverse cívica y también en la libertad lingüística

y hemos debatido sobre exámenes cualitativos de perfiles lingüísticos la evaluación del plan de normalización

dos mil ocho dos mil doce el plan de acción para la promoción del euskera

el plan general dos mil trece dos mil diecisiete el plan vasco de estadística y euskera señor isasi el debate monográfico

la memoria elebide dos mil trece la agenda estratégica euskera dos mil catorce las subvenciones

tema de las actas el tema de la memoria elebide dos mil catorce hemos hablado del euskera innumerables veces en educación en justicia

y además los presupuestos se van incrementando año tras año para ese esfuerzo

es decir la agenda estratégica dos mil trece dos mil dieciséis con sus ciento sesenta y ocho acciones más de trescientos treinta y cinco millónes de euros en su vigencia es decir este año

la dirección de política lingüística aumenta tres millónes de euros su presupuesto es decir no me diga que no se están dando

los esfuerzos necesarios que se está avanzado no dibuje ese panorama

igual le hacen caso iría contra

es que lo estamos viendo yo le he hecho una referencia a todo lo que se está trabajando en esta legislatura una colección es un resumen escueto de lo que se está haciendo

guías de fomento del uso del euskera aquí y en todas las administraciones forales municipales publicaciones cientos de publicaciones forales

las campañas las evaluaciones la campaña de euskaraz bai sano otras campañas en relación

los días del euskera patrocinados promocionados subvencionados

euskaltzaindia se referían antes el instituto etxepare el consejo asesor de euskera

las universidades las tres todas con sus planes de euskera y desde luego su promoción del euskera habe

señor isasi por favor no canse tanto hombre

si las cosas se están haciendo no nos aburra las cosas se están haciendo

pues bueno mejor o peor lo estamos avalando y algunas cosas nos parecen bien y otras las podemos criticar pero se están haciendo es decir no pinte ese panorama apocalíptico

desde luego es la herencia de herri batasuna la herencia de euskal herritarrok la que nos trae aquí esa estrategia pero yo creo señor isasi que es una estrategia equivocada

dos mil diecisiete plan de acción de promoción del euskera lo hemos visto en el trabajo del consejo asesor del euskera ratificado

y gipuzkoa cientos de planes municipales y además tenemos dinero para financiar al estado francés

literalki irakurri dizuet fundamentos de derechos esaten du vulneración eta karmelo barrio jaunak esplikatu duen moduan vulneración de los artículos uno dos tres cuatro cinco y seis de la ley

del uso del euskera en cuanto a la utilización del euskera

instaurado por el estatuto de autonomía del país vasco y por la citada ley

lotsa batere gabe idatzi du ese deber del conocimiento del idioma propio

no se compadece con el régimen de cooficialidad

por lo tanto es totalmente extemporáneo no

en cuanto a la referencia del señor urquijo lo que le pedimos

el que la iniciativa sea reiterativa porque es precisamente usted el que a menudo para justificar las

iniciativas que presenta dice que una iniciativa sea repetitiva así le hacemos recordar

su voto a favor a nuestra enmienda

señor azkue su enmienda de totalidad es una perogrullada porque precisamente

una enmienda de transacción y su enmienda a la totalidad

está trabajando por garantizar los derechos lingüísticos entonces no sé no le entiendo

gracias señora presidenta señor isasi o sea que

cuando los jueces se la niegan hay una confabulación del delegado del gobierno con determinados jueces en relación es decir la teoría del apocalipsis de antes mire los

mayoritariamente se la han dado en la inmensa mayoría de las ocasiones

en la inmensa mayoría de las ocasiones y además que funcionen los tribunales de justicia pues es el normal funcionamiento del estado de derecho es decir si alguien tiene una pretensión basada en la legalidad pues la puede exigir a los tribunales los tribunales decidirán es decir no hay que tener

tan grave es pedir a los ayuntamientos que redacten las actas en euskera y en castellano tan grave es o sea no solamente porque el delegado del gobierno tenga que recibir las actas o los ciudadanos que quieran leer las actas de los plenos

en euskera y en castellano tan grave es es que hacen

la normalidad jurídica y la normalidad administrativa no les voy a volver a leer el artículo ocho de la ley de normalización del uso del euskera

el delegado del gobierno mire señor isasi el gobierno este el vasco no ha considerado necesario modificar

hay un montón de normativa menor o reglamentaria órdenes decretos subvenciones no ha considerado necesario

que las cosas que sigue considerando necesario el artículo ocho de esa ley

pues usted ha presentado muchas iniciativas he estado haciendo un repaso

esta intervención muchas iniciativas

las mismas solicitudes de información solicitudes de comparecencia del señor baztarrika tiene que agradecerle a usted también que bueno

y de política lingüística usted ha presentado varias proposiciones no de ley

mociones preguntas de todo tipo usted presentó

un debate monográfico que se lo aceptaron debatimos presentamos propuestas de resolución un buen marco además para hablar de las cosas y hablamos y se hablaron y se votaron

de resoluciones ahí hay veintidós se las recuerdo veintidós resoluciones del pleno y del debate además fue en comisión el debate monográfico sobre

usted ha fracasado usted ha fracasado porque se le ha pasado una iniciativa

usted no ha pedido ninguna reforma ni ha planteado ninguna proposición de ley

y tiene capacidad usted para hacerlo y su grupo parlamentario usted ha hecho lo mismo que el gobierno infraactuar en materia legislativa es decir señor isasi
usted nos aburre pero usted no cumple con su obligación muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gaurkoan serantesko legez besteko proposamenarekin gatoz hay un principio que es de perogrullo las soluciones

más problemas que los que tratan de evitar con ellas pues este principio es absolutamente aplicable a la cuestión que traemos a debate hoy un debate en que lo que planteamos es claro y sin recovecos

el rechazo de la apertura del túnel de serantes hasta que no dispongamos de la variante sur ferroviaria

ortuella y barakaldo que se niegan a ser los paganos de anuncios electoralistas los paganos de una imposición más de un gobierno el de rajoy

porque de lo que hoy hablamos no es una metedura de pata más de la ministra de fomento ahora en funciones por cierto no es una decisión adoptada con alevosía

cuando la situación de la económica había dado un tremendo bandazo con la gran recesión y era evidente que el ministerio de fomento no iba a gastarse los seiscientos millónes de euros en que se presupuestó entonces

porque los municipios afectados se opusieron con buen criterio

si era a costa de que las mercancías pasaran por las zonas habitadas

dos hechos recientes han agitado las aguas por un lado a finales de noviembre

de la variante sur ferroviaria primera fase que incluye una variación sustancial respecto al proyecto originario en lo que se refiere

dando a los posibles afectados un plazo realmente exiguo de treinta días hábiles para presentar alegaciones

balitu en los estertores de su mandato el partido popular nos intentó colar una más como intenta colarnos la apertura de garoña si nos despistamos

imponiendo su mayoría absoluta como impuso la reforma laboral en contra de los intereses de los trabajadores como impuso la ley mordaza bueno pues a los vecinos de la margen izquierda y zona minera

un lugar específico el pp nos quería colar la apertura del túnel ya que sin atender a nada

y abrían el proceso del proyecto de la variante sur ferroviaria una propuesta que desprecia absolutamente a los vecinos de la margen izquierda y zona minera un proyecto que subestima y ningunea a los ayuntamientos de ortuella trapagarán barakaldo y bilbao

a los acuerdos que ya se habían alcanzado entre el gobierno de españa el gobierno vasco y los municipios afectados otra cacicada más del partido popular que incluso lo traen a la campaña electoral anunciado la próxima apertura del túnel del serantes

y sabiendo todo esto esta mañana la parlamentaria nerea llanos nos ha dado una lección y nos ha leído la cartilla a todos pero especialmente a los socialistas por pretender formar un gobierno y todo esto tienen a sus espaldas

no está justificado el impacto ambiental y además tampoco está justificado su coste legebiltzar talde honek

por tanto lo que presenta el ministerio qué

del pp para euskadi y en este caso para la margen izquierda y zona minera como hemos dicho antes es que

que estaban estudiando y trabajando en el compromiso del propio ministerio de fomento un compromiso que era doble los trenes de mercancías no deben atravesar los pueblos y no se puede utilizar la línea de cercanías que enlaza con barakaldo y entonces el gobierno se saca de la manga un parche utiliza la línea de cercanías cien dos abriría el túnel de serantes

y hasta que se desarrolle completamente la variante las mercancías pasarían por las poblaciones entre otras ortuella y trapagaran y mientras tanto

de barbaridad y que yo diría que partiendo de que es del todo inaceptable es un disparate y una salvajada un disparate y una salvajada

y no solo por el actual trazado sino por el importantísimo impacto natural ambiental y visual que va a sufrir el valle de el regato y también para bilbao donde se hipotecaría el futuro desarrollo de la zona olabeaga pues bien los socialistas nos oponemos frontalmente

y el estudio informativo con la conexión olabeaga que pretende realizar este gobierno interino

han mentido a vecinos e instituciones a las que hicieron creer que iban a acordar la solución nos oponemos a que los vecinos de

vayan a ser las víctimas de una de las últimas decisiones de la legislatura

y pedimos que este parlamento se sume a esa petición para que rajoy

con los ojos y oídos tapados laburbilduz

alderdi jeltzalearen izenean espero señorías que esta postura razonable y razonada cuente con el mayor respaldo de los grupos de esta cámara así lo espero yo

y ahora no sé si corresponde aquí pero sí me gustaría decir que hemos presentado en castellano

son dos lenguas oficiales pero creo que hay un error lo que hemos firmado dice trabajando en el desarrollo ejecución y adaptación de las infraestructuras

volvemos a tratar un asunto que ya hemos tratado en otras ocasiones en este parlamento como es el túnel del serantes y la conveniencia de poner en marcha

como digo es un tema recurrente el pasado doce de febrero de dos mil quince se celebró un pleno en el que el grupo socialista nos trajo una iniciativa

sobre la puesta en marcha de esta infraestructura el túnel del serantes el nuevo capítulo viene dado porque el ministerio de fomento ha sometido a información pública

primera fase el objetivo de este estudio consiste en valorar las diferentes opciones existentes en el recorrido para conectar la actual red

con el puerto de bilbao mediante el túnel del serantes

objetivo hacer la conexión también con la línea de alta velocidad que al parecer

y bilbao la opción que ofrecen consiste en realizar una nueva vía con una longitud de doce kilómetros para el transporte de mercancías con cuatro kilómetros de recorrido el túnel del serantes es el túnel más largo de bizkaia costó

durante casi un lustro entre dos mil cinco y dos mil nueve el motivo de que una infraestructura de este calado carezca por el momento de utilidad alguna

construido la variante sur ferroviaria una línea para trenes de mercancías que se diseñó pensando en unir el túnel con basauri

iría soterrada y que requiere de una inversión cercana

la idea de horadar el serantes y buscar una salida directa a los trenes con contenedores y mercancías

surgió hace más de dos décadas en el año dos mil

definitivo al túnel cuentan que el ex dirigente del pp

cuando descubrió que más del noventa por ciento de las cargas portuarias salían o entraban

por carretera según los últimos datos conocidos entonces en dos mil nueve los camiones

del tren esta estadística estos datos acabaron por convencerle de que había que descongestionar las autopistas

brillante pasaba por escavar cuatro kilómetros de corredor subterráneo para aflorar junto al barrio de nocedal en ortuella al otro lado del macizo costero

que debería ser totalmente remozada para soportar el tránsito de convoyes más largos y pesados durante los trabajos de ejecución del túnel se llegó al acuerdo interinstitucional con la participación de diferentes organizaciones sociales de que este

fuese una realidad con la posibilidad de que en caso de ser estrictamente necesario por algún problema en el recorrido actual pudiera ser utilizado de forma puntual y excepcional para dar salida a las mercancías del puerto de bilbao a través de ortuella y trapagaran

se conoció por los medios de comunicación que durante una reunión con la dirigente entonces del pp vasco arantza quiroga

anunció que el problema del túnel del serantes será resuelto de manera urgente solución

a través de la línea dos de cercanías renfe abriendo así la puerta a una supuesta ampliación

que costó a las arcas públicas cincuenta millónes de euros que pueden ir a la basura ya que no parece muy probable que la variante sur ferroviaria se vaya a realizar

por otro lado los efectos de que el noventa por ciento de las mercancías vayan por carretera son los siguientes pérdida de competitividad del tejido productivo

en el que la importancia de los costes logísticos es crítica al alargarse las cadenas intermodales y especialmente en nuestro país debido a su situación periférica dentro

ambiental por el uso masivo del modo carretera incremento de la dependencia energética de combustibles fósiles derivada de la baja utilización del sistema ferroviario sistemática degradación de la colaboración entre los modos de transporte y costes de la no actuación inasumible por los impactos generados en la baja sostenibilidad del sistema

siendo conscientes de que la apertura del túnel del serantes genera polémica en determinados municipios creo que es razonable proponer la apertura del dicho túnel ya que aporta valor añadido y una salida más segura de las mercancías del puerto

una inversión de cincuenta millónes de euros que efectivamente ya está

mientras que quedar a la espera de una variante sur ferroviaria totalmente externa a los municipios consideramos que es un brindis al sol de más de seiscientos millónes de euros la ministra pastor fijó el dos mil quince como año en el que se intentaría cerrar

de bilbao el gobierno vasco y los municipios implicados sobre el proyecto de la variante sur ferroviaria que permitiría dar salida al tráfico de mercancías desde el puerto vasco uno de los mayores anhelos de la autoridad portuaria efectivamente

el ministerio ha decidido afrontar el problema y darle una solución renunciando a obras faraónicas teniendo en cuenta la situación

nos parece a nosotros que es lo más razonable no podemos tirar a la basura cincuenta millónes estas son las razones fundamentales por las cuales no veíamos bien la iniciativa original planteada por el grupo socialista donde se nos pedía que este parlamento rechazara la propuesta de estudio informativo de la variante sur ferroviaria de bilbao realizado por el ministerio de fomento y también a través de la cual se nos pedía que este parlamento rechazara firmemente la puesta en funcionamiento

la propuesta original y tampoco compartimos la transaccional que ambos grupos han alcanzado

enmienda proponemos que este parlamento inste al gobierno de españa ha impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril a través de la adaptación a las necesidades del mercado aportando valor a la cadena logística global con objetivos de mejora de la gestión del sistema de la calidad del servicio de la eficiencia y de la sostenibilidad

el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructuras sean gestionados y puestos en marcha

una política expansiva de la burbuja de infraestructuras que solo ha generado en españa durante los últimos años despilfarro paro y corrupción por resumir y por decirlo gráficamente y por terminar mi intervención parece

que mientras existen también pasos a nivel sin barreras estemos planteando de una infraestructura de más de seiscientos millónes de euros lo que proponemos es que

y optimicemos las infraestructuras que hoy tenemos antes de impulsar obras faraónicas inasumibles para las arcas públicas es por esto como digo que rechazaré

y votaré a favor de nuestra propia enmienda gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildutik matute jauna zurea da hitza

en nuestra posición se encierra una enmienda a la totalidad una enmienda a la totalidad al

una enmienda a la totalidad a muchas de las políticas de transportes que se han venido realizando en el territorio histórico de bizkaia y más concretamente en ezkerraldea y meatzaldea fundamentalmente en ezkerraldea

son los efectos que han provocado todas ellas y lo que no vemos son los beneficios que nos prometieron que iban a devenir de todas ellas

de transportes que se han venido realizando sobre todo las que tienen que ver con los transportes de mercancías ya sea viaria o ferroviaria han sido vendidas como elementos de bonanza económica

y como elementos que iban a contribuir a una mejora de nuestro territorio en términos y parámetros económicos sociales y medioambientales la realidad es que todo eso es mentira o es directamente un fallo enorme por parte de quien lo planificaba se ha conseguido y lo explicaré a continuación y lo que vemos en la propuesta o estudio informativo que el ministerio de fomento realiza o realizó hace escasas fechas y que ha sido desglosada

impacto medioambiental y social más desprecio a la participación ciudadana a los ayuntamientos y a los movimientos sociales de los municipios la propuesta actual la propuesta que hoy estamos debatiendo aquí y que probablemente saldrá rechazada en función de la enmienda que

insuficiente pero que en cualquier caso debo reconocer que sí recoge ese rechazo lo que plantea es rechazar o lo que se puede devenir de ahí es un rechazo a unas formas insultantes impuesto un trazado impuesto para intentar dar sentido a una obra que carece de sentido el túnel del serantes cincuenta millónes de euros para hacer un hermoso agujero en un aún más hermoso monte

más allá de la de invertir cincuenta millónes de euros de todos y de todas en algo que no tiene uso

no creo que ni haga falta porque no creo que sea necesario acudir a esa comparación para entender lo absurdo del gasto realizado en un momento determinado

pero también creemos que es impuesto y que se impone para llevar adelante el proyecto de la y vasca y yo cuando tenía este punto temía que alguien me dijera

que es que aprovecho temas concretos para hablar de las lecturas globales y de nuestra cosmovisión de las cosas que suele ser bastante contraria

que ha hecho un repaso por la toda la cadena de perversiones del partido popular con la que estoy bastante de acuerdo

con lo que creo que mi conexión argumental entre

de trazado ferroviario y la y vasca no va a quedar en absoluto extemporáneo y además voy a intentar explicar porque es de todo punto pertinente

que necesita una conexión santander bilbao que creo que le va a costar muchos kilos y kilos de anchoas a revilla poder llevar a la práctica porque creo que las arcas

y quizás en eso aunque nuestra posición política haya sido previa y clara al respecto

por la precaria situación económica en la que se encuentran las arcas del estado y no tan holgada las arcas vascas es probable que ese trazado de alta velocidad

pero en cualquier caso lo que no entendemos es que se quieran tapar chapuzas anteriores como la del tren del serantes y como todas las anteriores porque yo invitaría a sus señorías

a que entendieran que la orografía es complicada pero

hasta ver un territorio mallado un territorio lleno de cicatrices de cicatrices ferroviarias

un territorio que no puede estar compactado que no puede tener núcleos urbanos compactados porque está atravesado directamente por infraestructuras

por núcleos urbanos y que además lo hacen no de manera soterrada como piden muchos de los ayuntamientos de la zona sino

en superficie esa es la realidad y por eso décimos que no creemos que la solución sea tapar chapuzas con chapuzas

relativamente bueno o relativamente malo pero que en cualquier caso ayudaría siquiera a paliar un poco la situación actual esto es directamente otra chapuza otra chapuza que también se puede cuantificar porque aquí se habla de macro infraestructuras o de despilfarros dónde está el límite que señala cuándo una macro infraestructura es despilfarro o cuándo no lo es yo sé que trescientos diez millónes de euros trescientos diez millónes de euros que es lo que cuesta este proyecto no es desde luego una obra menor no es una obra menor ni una obra doméstica parece una obra de cierta envergadura lo parece

y también por la insistencia de quienes nos oponemos a determinadas líneas de actuación sobre el urbanismo como la que ustedes plantean no es en absoluto

para intentar vendernos otra vez la moto y lo digo así vendernos otra vez la moto de que se necesita tanto dinero para sacar todas las mercancías del puerto de santurtzi porque ahí también se miente se dice que en el año dos mil catorce hubo un incremento del trafico de mercancías en el puerto de bilbao en el puerto que está en santurtzi conocido como el puerto de bilbao

un incremento del dos coma cinco por ciento lo que no se dice lo que se oculta

hubo un descenso del veinticinco por ciento en la entrada de mercancías al puerto de bilbao al puerto de santurtzi esa es la realidad

ustedes muchos de ustedes siguen haciendo fotos que tienen que ver con una realidad ya pasada yo no sé si caduca pero desde luego ya pasada no estamos en los volúmenes de mercancías de hace quince años

y probablemente se empeñan en llevarlos adelante aunque cuesten una millónada porque el dinero no es suyo o lo es en una muy pequeñita parte

que no nos consultan del todo pero claro hablábamos del carácter de cicatriz

de ezkerraldea y meatzaldea y yo no quiero olvidarme de la supersur

que iba a solucionar todos los problemas de tráfico de mercancías

es la que es y es bastante triste porque no hay rentabilidad económica y no hay rentabilidad social porque el uso de la supersur no alcanza el cuarenta por ciento del previsto

es decir que consiguiendo que haya conectividad a internet entiendo

yo no sé lo que pensará tráfico de esto pero no me imagino que mejorar la conectividad sea lo más adecuado para incrementar

no se utiliza y como le decíamos esto

con la y vasca con una y vasca que también lo dice otra gente no lo décimos nosotros ni siquiera lo dice gente de los trazados de alta velocidad no va a recuperar ni los costes de inversión

esa es la triste realidad de un empeño en seguir manteniendo infraestructuras que en la actualidad no son necesarias que nosotros creemos que no lo eran antes pero que desde luego en la actualidad por la realidad cambiante de nuestro país no lo son y por eso planteamos la iniciativa que planteamos porque estamos en total desacuerdo de los impactos sociales que va generar en santurtzi portugalete sestao barakaldo ortuella y trapagaran o olabeaga por citar solo algunos

se quiere acordar ahora de una realidad que será bastante dramática si se da quieren atravesar

con un túnel esa misma celda de lindane la de argalario en diez años

que quitarse todo ese suele de ahí porque ya habrá cumplido su función qué van a hacer entonces con el túnel va a pasar otra vez a ser

un túnel que deja de ser un túnel y se convierte en un trazado otra vez a ras de suelo es un completo disparate y por eso planteamos la propuesta y la mantenemos y no estamos de acuerdo con la iniciativa

todas la grandes obras se sigue adoleciendo de una lectura muy clara

parece que no consideran imprescindible queremos ser muy europeos queremos ser punta de lanza en europa a veces comparados con los del norte de europa las más de las veces pero sin embargo

va redundar en beneficio de todos y todas en virtud o en función

no se quiere contemplar nos parece un sin sentido y nos parece que sin analizar esta cuestión todo lo que hablemos aquí pues volverá a ser lo de siempre un debate entre
lo que algunos querrán tildar como desarrollistas y no sé si nosotros como primitivistas besterik ez mila esker eskerrik asko matute jauna

legebiltzar honetan eta hiru aldietan talde berdinagatik talde sozialistak y la verdad es que tratar un asunto

la verdad es que produce una cierta fatiga intelectual aunque también por otro lado a nuestro juicio puede ser indicativo

en esencia podríamos remitirnos señorías a lo manifestado en el pleno celebrado en esta cámara

y dar por reproducido los argumentos entonces utilizados en aquella ocasión fueron una declaraciones de la ministra de fomento en un foro económico celebrado en bilbao las que motivaron la iniciativa esta vez ha sido las declaraciones de la misma ministra de fomento en funciones de un gobierno en funciones

en ambos casos se refería a la posible apertura del túnel de serantes

a nuestro juicio no debiera haberse dado más importancia al asunto que es una declaraciones políticas realizadas en campaña electoral por un gobierno en funciones

en la cámara pues como se ha dicho que el ministerio de fomento a finales del pasado mes de noviembre ha publicado el anuncio por el que se somete información pública del estudio informativo de la variante ferroviaria primera fase a los efectos de audiencia a las

y el trámite de información pública establecido en la legislación ferroviaria y ambiental aplicable al caso al objeto de que puedan formularse

creo que todos los grupos coincidiremos en apreciar la importancia del tráfico de mercancías en nuestra sociedad

en particular el transporte de mercancías en una sociedad industrializada

puesto que contribuye a la productividad económica y a la generación de ingresos y lo hace efectivamente más que el transporte de personas

en este caso se trata de facilitar el transporte de mercancías por ferrocarril

de santurtzi o bilbao a otra áreas industriales tanto próximas o alejadas del mismo

además del puerto existe otra zona que conforma un gran movimiento de mercancías tanto en origen como en destino aunque sobre ella

se pretende con ello solventar los problema de congestión de tráfico de mercancías por carretera

se está incrementando con motivo de la actividad portuaria y cierto es señor matute que efectivamente en el periodo dos mil siete dos mil once

dos coma uno por ciento en el año dos mil trece un cuatro

pasado dos mil quince a decir verdad la organización ferroviaria en euskadi lleva estancada muchos años por motivos políticos

es una infraestructura necesaria para facilitar el tráfico de mercancías como digo

en la iniciativa original presentada por el grupo socialista observamos una contradicción entre los puntos uno y cuatro no sabíamos si estaban o no de acuerdo con la construcción de esta variante sur ferroviaria

presentada porque muestra su rechazo como digo a la propuesta de estudio informativo

variante sur ferroviaria debe construirse en segundo lugar rechazaba firmemente la puesta en funcionamiento del túnel de serantes y nosotros entendemos que esta infraestructura ya construida

suscrita nuestro grupo quiere poner el énfasis no tanto en las declaraciones de la ministra realizadas con más o menos fortuna sino en los hechos producidos

una propuesta que nos parece acertada en líneas generales aunque existan aspectos que es posible mejorar sobre los aspectos de mejora del trazado ya el gobierno vasco ha realizado

y la conocen todos los parlamentarios porque ha sido remitida a esta cámara ante una petición de información de un parlamentario concretamente

al soterramiento del trazado a su paso por el municipio de ortuella asimismo

la modificación del desplazamiento hacia el sur del viaducto sobre el río castaños que permita

a la zona deportiva del barrio gorostiza y lo mismo

olabeaga y que se propone que se soterré de modo que con estas propuestas lo que se pretende es evitar o minimizar los potenciales

crecimiento de los respectivos municipios además de otras medidas para minimizar el impacto nuestra postura sobre la variante

presentada y que ha servido de base para alcanzar un acuerdo con el grupo socialista al que agradecemos los esfuerzos realizados para alcanzar el citado acuerdo y que someramente paso a desgranar

para concretar en el territorio las decisiones políticas en materia ferroviaria mediante la utilización de las herramientas de planificación territorial

en nuestra comunidad autónoma a continuación planteamos que se construya la variante sur ferroviaria y que se utilice una infraestructura

en tercer lugar que se analicen y resuelvan las alegaciones que puedan presentarse atendiendo fundamentalmente a los aspectos ambientales que plantea el proyecto que se pretende realizar y finalmente proponemos

y todo ello con independencia de que sigamos reclamando la transferencia de medios

prevista en el estatuto de autonomía de gernika y que ha sido largamente incumplida por los respectivos gobiernos de la administración general del estado como explicó ayer mismo nuestro lehendakari

la iniciativa de eh bildu porque se propone radicalmente a cualquier solución ferro portuaria en esta zona y respecto a upyd

se refieren a criterios generales y a cualquier planificación de infraestructuras de transportes está bien pero es vacua no dice nada por eso nos mantenemos en la propuesta sobre la que hemos alcanzado un acuerdo con el grupo socialista al que de nuevo quiero dar las gracias por la

señor elola probablemente esté un poco

usted porque el tono de la intervención del portavoz nacionalista

al entusiasmo en su intervención demonizadora de lo que ha sido el gobierno del partido popular en estos años pero bueno aun así está de enhorabuena porque ha conseguido firmar

pero yo tenía hasta curiosidad intelectual por ver el derrape del partido nacionalista vasco en esta materia teniendo en cuenta todo el proceso que hemos vivido y toda la intrahistoria en este

pero bueno la cuadratura del círculo existe y eso es la enmienda transaccional que hoy saldrá adelante bien esta misma semana hemos conocido datos

relativos al puerto de bilbao ha sido un seis por ciento el aumento del tráfico de mercancías en dos mil quince

uno coma ocho millónes de toneladas más con respecto al dos mil catorce ese dato no lo tenía actualizado el señor matute el puerto

en la ruta atlántica para acceder al mercado europeo el gobierno de españa en esta legislatura pidió a bruselas financiación para ejecutar sesenta infraestructuras de transporte y el primer proyecto de la lista era el de la mejora de la conexión ferroviaria del puerto

era importante incluso urgente desbloquear el proyecto de la variante sur ferroviaria para acabar con el cuello de botella que producen las actuales conexiones ferroviarias pero es que esta importancia

esta importancia llevamos ya décadas arrastrando con la incapacidad

solución a esta situación la solución es la variante sur ferroviaria una demanda fundamental de la comunidad portuaria de bilbao desde hace ya muchos años el ministerio de fomento y su titular la señora pastor

informativo de la variante en dos mil quince algo por lo que se felicitaban también los responsables del gobierno vasco del partido nacionalista vasco

desde luego la ministra y aquí no se lo he oído decir a nadie ha cumplido su compromiso y en noviembre esto era una realidad fomento sometió a información pública el estudio de la variante sur ferroviaria de bilbao la primera fase

de trazado para poner en servicio el túnel ferroviario

construido pero inutilizado desaprovechado

de euros bien la información pública lo es también a los efectos medio ambientales ya que la presente actuación se

al procedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado por la ley de evaluación ambiental y previamente a su aprobación definitiva se requiere la formulación de la declaración de impacto ambiental por el ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente se han estudiado tres alternativas de trazado que conecta la boca sur del túnel de serantes

acompañados en su caso de duplicación parciales de la línea ce dos la alternativa propuesta consiste

se produciría en el apeadero san mamés en el barrio de olabeaga

así como dos viaductos con esta solución se independizan los corredores de cercanías y mercancías evitando

este estudio se ha expuesto en la subdelegación del gobierno de bilbao en la secretaría de infraestructuras en madrid en los ayuntamientos de bilbao barakaldo

poderse consultar a través de la web del ministerio se han presentado alegaciones a este estudio por parte entre otros del gobierno vasco que es a quien este parlamento debe controlar su acción e instarle a tomar iniciativas

alegaciones del gobierno vasco tienen por objeto reducir el impacto de las infraestructuras en puntos concretos y potenciar los usos y la funcionalidad de la variante ferroviaria desde el ministerio se tendrá también que considerar la conveniencia de modificar la propuesta de adif

bajo el tronco principal del acceso viario ejecutado en bilbao desde

es cierto que de esta manera al quedar totalmente cubierto se respetaría los planes de usos residencial en la zona previstos por el ayuntamiento de bilbao en su plan general de ordenación urbana el gobierno vasco también ha propuesto cambios para ortuella y para barakaldo

aquí en el seno del parlamento vasco este es el foro y no

tampoco es el senado tampoco somos los plenos municipales de las localidades afectadas que ya han podido presentar sus correspondientes alegaciones entendía que todos los grupos

pero a estas alturas del debate y de la historia ya tengo

y consideraba también que todos queríamos que se hiciera

con las menores incidencias posibles para los vecinos y municipios afectados

imposible que haya cero afecciones y que comprendiendo a todos y cada uno de los municipios se impone también tener una visión de conjunto que combine aspectos presupuestarios medioambientales urbanísticos cronológicos políticos y competenciales y aquí si somos honestos todos y unos más que otros

a la última polémica de turno al último debate parlamentario de turno sino que lo hacemos con perspectiva histórica

que haya ningún partido de los aquí representados que haya sido capaz de cuadrar el círculo en cualquier caso nada es todavía definitivo las alegaciones todavía no se han resuelto se está analizando y veremos si hay capacidad para llegar a un mayor consenso

y espero que así sea desde luego en ello se está trabajando tanto desde el partido popular como desde el gobierno de españa en cuanto a la iniciativa original claro está no la vamos a apoyar y además con la

nos parece que no contribuye a avanzar en esta infraestructura en la solución al problema de las mercancías del puerto y que se está poniendo la venda

en las localidades afectadas y porque ustedes parece que van a continuar retrasando

en este parlamento me concederán que ha cambiado sustancialmente de cariz y bueno por lo menos a la hora de intervenir el partido nacionalista vasco ha tenido la prudencia de no sumarse como he empezado en mi iniciativa al entusiasmo demonizador del

creo y también creo que el tema de la variante ha pasado a un segundo plano y que probablemente dado

son otros las premisas que prevalecen gracias

ha tratado mi intervención de demonizadora y se ha sorprendido

y el que quiere sumarse se suma luego no imponemos nada

que hayamos hablado de imposición de cuatro años de legislatura

se ha tratado de esa manera y es por eso que ustedes el partido popular

él solo dice que no se ha hablado o que se ha dejado la variante en segundo plano yo creo que ha estado en la intervención en todo momento en la mente de todos por lo menos en la nuestra y si no está aquí en la transaccional

quizás estaba tan claro lo que decíamos que no hacía falta repetir

el señor oscar matute efectivamente

que rechaza las formas insultantes en que se han tomado las decisiones en cuanto a la decisión

la señora ruiz igual no sea enterado pero hemos tratado hemos tratado y hay un proyecto que no está realizado

y si usted se ha dado cuenta nosotros hemos dicho que sí estamos a favor de esa variante tal cual está que está todo para debatir y como ha dicho que se ha tratado de una forma insultante a los vecinos he entendido yo le voy a leer por si no ha leído el tercer punto de la transaccional que estaba en las

podremos hablar de eso y como no andamos muy bien de tiempo pues voy a continuar efectivamente

no no yo le he agradecido a usted porque era nuestra propuesta

pero encima parece ser que hemos ido de su mano no

ha dicho tres veces ha sido traído por el partido socialista este tema quizás estén faltos de temas para venir aquí mire le recuerdo

en el cuarto punto hablando de la acción del gobierno vasco el señor pastor ya les ha dicho todo lo que se ha ejecutado cuántas leyes se han hecho cuántas a propuesta del gobierno y cuántas a propuesta del resto de grupos de la oposición y cuántas a propuesta del partido socialista

y la razón por la cual hemos traído esta proposición ha sido precisamente porque es preocupante y porque los vecinos

el partido popular a través de su ministra y de algún miembro del partido popular en esa línea hemos traído precisamente porque nosotros recibimos

que con sus enmiendas se ha reforzado la propuesta no con sus enmiendas como con las nuestras hemos llegado a una transaccional que de alguna manera es más fácil de entender

aquí en este parlamento ha defendido lo mismo que en juntas generales lo mismo que los ayuntamientos lo mismo que en el senado y lo mismo que en el congreso vamos a defender lo mismo

y lo que tiene que quedar claro es que estamos en contra

el resto dice lo mismo nosotros ahora sí mientras no se concrete y no se aclare

estamos en contra de cualquier posibilidad de que cualquiera de los trenes pase o atraviese los pueblos antes mencionados estamos en contra el resto sí el partido popular sí y por supuesto

señor matute estamos en contra y vamos a apoyar que cualquier decisión que se tome

por los pueblos de alguna manera afectados eskerrik asko elola jauna

como dicen que cinco minutos justos así que no me voy a pasar ni un segundo voy a más velocidad de la que habitúo

todo puede haber pero yo no he dicho yo no he señalado las maldades y el carácter impositivo y las formas a su texto a su enmienda

venía caracterizado por ser absolutamente impuesto

que yo no les he imputado que puedo no estar de acuerdo con su iniciativa y creo que he explicado por qué pero no era exactamente por eso

no se trata de que la decisión que se tome sea tenida en cuenta por los ciudadanos

es que lo que se decida tenga en cuenta lo que los ciudadanos y ciudadanas están opinando lo que los ayuntamientos

pero también queremos dejar clara una cosa y nos parece preocupante en este debate en algunos ayuntamientos de la zona en algunos partidos políticos que ahora tienen una posición de preeminencia en los ayuntamientos de la zona

no porque me parezca mal que al vecino le destrocen el territorio que se lo mayen con costuras y con cicatrices sino porque ahora me toca a mí o porque ahora gobierno yo y porque ahora yo no quiero hacer frente a una realidad social que molesta a quien incomoda eso a nosotros no nos gusta demasiado

ustedes ahora sí decía nosotros ahora sí estamos en contra del túnel de serantes eso es como el de entrada no de la otan

no estábamos a favor del inicio de las obras del serantes no estábamos a favor

nacionalista vasco también no nos oponemos a cualquier solución ferro portuaria yo creo que en este debate como en todos conviene y es bueno hacer una cierta cronología

como respuesta a la necesidad de dar salida a las mercancías del puerto de bilbao fundamentalmente

la plantearon ustedes y la plantearon ustedes porque priorizaron priorizaron

el vehículo como el instrumento o canal que diera salida a las mercancías del puerto de

no fuimos nosotros luego si alguien hizo una jerarquización que dejó atrás a la solución ferro portuaria fueron ustedes

más que discretos en cuanto a lo que iban a ser las ventajas que iba a obtener pero eso nuevamente es responsabilidad de quien proyecta a los ojos de los ciudadanos y las ciudadanas una realidad que luego nunca se cumple y esa es verdad

podríamos hablar también de las estimaciones que se hacían para el puerto de pasaia para el puerto exterior de pasaia se hablaba de veinte millónes de toneladas año la realidad es de tres coma ocho

pues parece que esa necesidad imperiosa para construir el superpuerto en ese caso

no era tanto en función de la realidad y eso es una dinámica una constante que se viene produciendo en todas las grandes obras y que hace que nosotros vengamos pidiendo y por eso

sea consciente de que cuando hablamos de gastos importantes de gastos muy importantes es necesario que contemos con las máximas garantías posibles aceptando un porcentaje de improvisación

para que sepan los ciudadanos en qué se está gastando y cómo le va a revertir lo que se está gastando porque lo que no puede ser es que sigamos haciendo macro infraestructuras

pero unas facturas que luego siempre tienen que pagar esa es la realidad con la que venimos viviendo y es una realidad en la que tampoco vemos que en este debate se le vaya a dar solución

las alegaciones que han hecho los ayuntamientos y los colectivos sociales tanto de barakaldo como de meatzaldea como del resto de la zona se dará cuenta de que se quejan del escaso tiempo que se le ha dado del carácter bastante irreal de algunas aseveraciones que se hacen en el estudio informe y lo que no plantea en ningún caso es que se le haya dado un margen para el consenso cuesta creerlo sin necesidad de entrar a demonizado más a un partido esencia de gobierno que se ha demonizado por sí misma ya se lo han recordado aquí parece que no hace falta recordar que son

poca audición poca escucha atenta a lo que dicen los ciudadanos y ciudadanas

señora cristina ruiz nosotros no hemos

de definir mediante un proyecto la solución a este problema que nos encontramos en esta zona y con estas infraestructuras por tanto derrape ninguno

sí le agradezco que me haya corregido los datos respecto al aumento del tráfico de mercancías los datos eran de tres coma cinco por ciento usted ha dicho que el seis por ciento y en fin

y en este asunto sí que es cierto señora ruiz nosotros debemos de reconocer el esfuerzo que el ministerio de fomento ha realizado al respecto en orden a definir una solución

que ocultar respecto al grupo socialistas

perfectamente claro que nosotros no apoyamos la apertura del túnel de serantes de hecho así aparece recogido expresamente por tanto no hay nada que objetar al respecto con su

se profundizaba a nuestro juicio en el estancamiento histórico que impide la modernización

en esta cámara su preocupación por meatzaldea y ezkerraldea en esta materia la verdad es que nos suena un poco

solapándose con tres y medios del gobierno del señor lópez y no han hecho absolutamente nada lo único

redactado entonces y lo único decirles que si consiguen formar gobierno

pero no sé si deben estar muy convencidos a ellos por la iniciativa que nos han traído hoy aquí en orden a discutir con el partido socialista

aprovechando cualquier circunstancia respecto a bildu

pero en el estudio informativo como decía todas esas cuestiones sobre el costo previsiones de tráfico costo de construcción etcétera se contienen en el mismo se podrá estar de acuerdo con él

discutir ciertamente nos parece un poco paradójico que ustedes primero

análisis de coste beneficio el coste beneficio para qué de algo que ya están inicialmente dispuestos a no aceptar entonces en fin creemos que el proceso intelectual en esta materia debe de ser al revés primero tener información

pedir estudios ustedes lo que tienen que hacer es posicionarse señor matute sobre esta problemática creen ustedes que la red convencional existente las líneas cien uno y cien dos sirven para soportar el tráfico ferroportuario o creen que no hay que hacer nada que es suficiente con lo que hay nosotros

la planificación territorial tanto que ustedes vienen devanando una y otra vez

decisiones políticas sobre tráfico de mercancías ustedes

nosotros la practicamos inclusive hubo un tiempo en que ustedes desde el gobierno también la practicaban junto con nosotros

ferroviario ustedes estaban en el gobierno apoyaban de una manera u otra

tienen acuerdo el pnv y el partido socialista pero en el espíritu no he visto yo excesivas complicidades me parece que ha sido un poquito un poquito forzado este acuerdo esa es mi impresión pero claro

y estamos en un momento en el que hay un gobierno en funciones y algunos deben creer que a perro flaco y de flaco nada que esto no son pulgas

reclamando la competencia sobre los servicios ferroviarios y la gestión de la red de adif

el pnv y el partido socialista a diferencia de lo que pasaba cuando debatimos por última vez en coalición desde mayo en gobiernos municipales ha habido también cambios de colores políticos también hay acuerdos presupuestarios

de pedro sánchez yo creo que todo esto también contribuye a hacer que sea una enmienda y un debate como el de hoy porque sino difícilmente se entendería las palabras y los reproches que se intercambiaban en este mismo parlamento en esta misma legislatura cuando el partido nacionalista

que luego se quedaban en el sueño de los justos que ha tenido que llegar un gobierno del

vuelva a coger ritmo que es evidente que partimos de

radicalmente distintos con el grupo socialista que en fin con el planteamiento socialista no se consigue nada

esto seguimos teniendo el monumento al túnel también se hablaba de facilitar el cumplimiento de compromisos socialistas de antaño

santurtzi de la utilidad social y de la rentabilidad de los más de cincuenta millónes de euros invertidos en el túnel del serantes sin propiciar su apertura

todo esto se lo decía el partido nacionalista vasco hace unos meses en este mismo parlamento yo no llevo tanto tiempo de

por eso entiendo que las cosas o se contextualizan mucho o no se entienden y

matute que no escuchamos a la margen izquierda y a la zona minera

no sé supongo que su compañero el señor casanova le tiene al corriente de los trabajos de la ponencia

y no hace tanto que yo le he escuchado a la alcaldesa de santurtzi y yo no sé si suscribiría

en esa ponencia pero en fin igual estamos hablando

muy diferentes y desde luego este debate no es tan maniqueo como se pretende y usted mismo ha hecho referencia yo ahí estoy completamente de acuerdo

vamos con lo que ha costado esa infraestructura el gobierno vasco si tuviera la competencia podría bueno no solo

con ese presupuesto así que bueno esto debe ser algo de lo de la agenda vasca ahora lo entiendo me ha costado pero ahora entiendo lo de la agenda vasca y yo supongo que de esto están hablando en sus mesas de negociación y en sus

que ahora sí sean ustedes capaces de por lo menos de bueno seguir manoseando esta quimera en la que

adjudicar responsabilidades a quienes nos hemos esforzado por sacar adelante un proyecto y a quienes simplemente se han dedicado
a traer debates parlamentarios pero sin avanzar un ápice a diferencia de nosotros gracias eskerrik asko ruiz andrea eztabaida amaitu denez